egun on guztioi lehendakari egun on nuestra pregunta de hoy es relativa a las prioridades presupuestarias del ejecutivo que usted

y la creación de empleo neto el día trece como usted ha dicho señora gorospe

y sobre esta base el consejo de gobierno aprobará el proyecto de ley de presupuestos el día veintiuno de febrero esa es nuestra intención compartimos una prioridad más y mejor empleo reducir la tasa de paro por debajo del diez por ciento

para lograrlo vamos a aprobar un nuevo programa marco de empleo y reactivación económica

hasta el año dos mil veinte este es el programa más ambicioso y completo que se ha desarrollado en euskadi en apoyo al crecimiento sostenible completo también en la generación de empleo esta es la prioridad del gobierno el eje central sobre el que se asienta nuestra política económica pública este programa marco se basa en la experiencia adquirida desde septiembre del año dos mil trece

apoyar la formación para el empleo el emprendimiento y el empleo juvenil

que sustenta un crecimiento futuro sólido y sostenible euskadi es hoy un país en crecimiento y nuestro compromiso es consolidar esta tendencia de forma que mantengamos por una parte el crecimiento sostenible a través de la reactivación y el empleo de calidad

igualdad y servicios públicos de calidad no cabe duda de que se mantienen las incertidumbres en nuestro entorno nuestra mano está tendida para concentrar los esfuerzos

crecer y consolidar la senda de creación de empleo en un contexto de recuperación progresiva de la actividad económica vasca en todos los sectores

eta garbi zero tolerantzia dice usted señora etxebarrieta como si fueran cuestiones anecdóticas pues mire quiero subrayar que el gobierno está actuando en relación a los abusos

por no considerarlos precisamente anecdóticos empleo y políticas sociales con el teléfono de atención a la infancia y adolescencia

una iniciativa en marcha desde el quince de noviembre en la que participan todas las instituciones y entidades implicadas emakunde el programa de prevención de beldur barik protocolo contra el acoso

guía de actuación para profesionales de servicios sociales servicio de defensa y asesoramiento señora etxebarrieta

del lehendakari en relación a esta cuestión es de tolerancia cero eskerrik asko

en cuanto a mi declaración en roma es importante insisto conocer su contexto se me preguntó si tenía previsto con el secretario de estado del vaticano atender la situación del exvicario general de gipuzkoa y a esto fue

el abuso sexual al igual que la explotación sexual la pornografía infantil la trata con fines de explotación sexual el turismo sexual son formas de violencia que atentan contra su integridad psíquica y emocional

los abusadores esto debe quedar muy muy claro no son enfermos son la expresión de una sociedad adultocéntrica y patriarcal que abusa y cosifica y mercantiliza a la infancia

acusación particular en el supuesto que lo consideren las víctimas con las que aún

comparto el criterio de realizar la investigación en el ámbito judicial y respeto también el derecho de las víctimas a preservar el anonimato

adoptada esta decisión nos corresponde respetar la investigación antes de tomar ninguna iniciativa sobre el posicionamiento del gobierno vasco en el proceso judicial reitero que mi prioridad en este asunto son las personas afectadas y sus familias

nuestro deber es proteger a estas personas y darles nuestro apoyo por lo que han sufrido y la situación en que viven eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna arana andrea

sin embargo hay numerosas otras medidas que corresponden al gobierno vasco y que son imprescindibles para avanzar hacia una sociedad libre de violencias hacia la infancia y la adolescencia

del niño o la ley de atención y protección a la infancia y adolescencia de garantizar el ejercicio de los derechos recogidos en la normativa internacional y nacional esta última

especial consideración a los casos en los que los niños niñas o adolescentes sean víctimas de delito y adoptar las medidas de apoyo y protección que resulten más adecuadas y perdóneme señor urkullu sus medidas de apoyo en este caso

desde elkarrekin podemos creemos que es fundamental fortalecer el observatorio de infancia y adolescencia se necesitan

necesitamos trabajar más y más contundentemente en la prevención y en la sensibilización social y la detección precoz la atención integral debe generar procesos

de vida libres de violencia debe preocuparnos y ocuparnos garantizar el derecho al acceso

el mundo adulto sigue poniendo en duda la palabra de niños y adolescentes más aun cuando señalan a personas en la mayoría de los casos varones que tienen un lugar de autoridad en el ámbito familiar

hay numerosas situaciones que no llegan a ser denunciadas en sede policial o judicial y cuando son denunciadas la palabra de niños niñas y adolescentes

es elevada demostrar un abuso sexual es un camino realmente doloroso debemos impulsar un enfoque que ponga la palabra y las necesidades de niñas

hay muchísimo por hacer señor lehendakari y pretendemos profundizar mucho en esa temática durante esta legislatura proponemos y ya lo propusimos al principio de esta legislatura trabajar en diversas iniciativas que una de ellas ya adelanto que ya se la propusimos

que probablemente o desgraciadamente puedan salir más casos y creemos que hay que poner este tema en el punto

yo le voy a decir nuevamente lo que estamos haciendo estamos haciendo en empleo y políticas sociales con el teléfono de atención a la infancia y adolescencia

y atención en los centros escolares una iniciativa en marcha desde el quince de noviembre en la que participan todas las instituciones y entidades implicadas estamos haciendo desde emakunde con el programa de prevención beldur barik

con la guía de actuación para profesionales de servicios sociales con el servicio de defensa y asesoramiento

proponer otras iniciativas otras medidas en el caso de que se constituya la comisión de infancia y juventud está en su perfecto derecho nosotros estamos haciendo desde el gobierno y le reitero lo dije el primer día y le reitero hoy en el caso concreto como en todos los casos tenemos que respetar la situación de todas las personas que han denunciado el acoso

es una cuestión en la que los propios afectados tienen la vía judicial para hacer su propio recorrido

y no nos corresponde señora arana ser acusación particular se equivoca usted en ese planteamiento

preservar su anonimato y yo lo respeto y si en algún momento solicitan reunirse con el gobierno vasco estaremos sin ninguna duda dispuestos a atenderles

mi respuesta como representante institucional y mi postura

y que nos corresponde respetar sus tiempos no nos corresponde ser jueces

por estos hechos y nuestro compromiso con la prevención y la ayuda a través de programas específicos del gobierno vasco como los que está implementando y reitero también que en el caso de que las familias así nos lo soliciten manifestamos nuestra disposición a contribuir

y se tomen las medidas oportunas nuestro objetivo es conseguir algo que creo que deseamos todos y compartimos todos que estos hechos

que la ley de vivienda ha sido un hito reciente en la ampliación de derechos para los vascos y vascas es algo que a estas alturas creo que queda perfectamente claro impulsada y trabajada por los socialistas vascos desde la firme convicción de que la igualdad la solidaridad y la justicia social como herramienta de progreso hacia una sociedad con mayor

impulsada poniendo en práctica hasta la última de las posibilidades que nos ofrecen nuestras competencias para afianzar esos principios y en este ámbito teníamos precedentes a la propia aprobación de esta ley no fue una ley oportunista al calor de unas circunstancias dramáticas

a las hipotecas a las que se habían encadenado la ley estaba pensada de antemano estaba siendo trabajada en medio de esas tareas que tardaron en culminarse más de una legislatura desde el gobierno socialista y que miraron las posibilidades a nuestro alcance para dar respuestas inmediatas que evitaran ese desalojo claro ejemplo de ello fue

en marcha de la oficina antideshaucios que coordinó la entonces consejera de justicia idoia mendia junto con el departamento de vivienda que dirigía el entonces y actual consejero iñaki arriola y el departamento de consumo que aquella fue una experiencia de éxito porque nunca será un éxito total saber que hay familias que llegan a ese límite que se ven en riesgo de verse fuera de sus casas

diré que fue una experiencia que ofreció soluciones que evitó

el vértigo muchas familias fueran expulsadas de sus hogares por razones sobrevenidas no porque hubieran

como tantas veces se nos repitió no fue un éxito pero en cambio sí fue un ejemplo primero para quienes después constituyeron otros proyectos políticos que tanto criticaron al socialista y que acabaron tomando

para otras administraciones que tomaron como ejemplo y como espejo nuestra experiencia y la tomaron como suya poniéndola en práctica pero es evidente

todos los medios a nuestro alcance surgen nuevas casuísticas a las que se debe seguir ofreciendo soluciones señor consejero este mismo lunes usted nos habló de un nuevo protocolo para impedir el desalojo de las familias

de alokabide en qué situación se encuentra dicho protocolo eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

gracias presidenta señor andueza nuestro departamento a través de la sociedad pública alokabide

de alquiler al margen del programa asap

con datos de dos mil dieciséis pagaron una renta media mensual

euros dado que se trata de una renta social equivalente al treinta por ciento de los ingresos ponderados de las familias este dato evidencia

reducidos quiero dejar claro que la inmensa mayoría de los arrendatarios cumple puntualmente con sus obligaciones

alokabide cuenta con un importante equipo en el área social que atiende a las personas e intenta buscar la solución aplazando pagos

a las circunstancias sobrevenidas alokabide actúa siempre de forma garantista pero a pesar de ello se dan casos

que unidos en ocasiones a problemas de convivencia traen como consecuencia el inicio de procesos judiciales de desahucio y en último extremo el lanzamiento de la vivienda así

a cuarenta y seis viviendas lo que supone el cero coma treinta y ocho por ciento del parque de alokabide no es una cifra elevada pero estamos tratando con personas

por eso nuestro objetivo es reforzar todavía más las garantías para que ningún inquilino de alokabide que sea deudor de buena fe acabe perdiendo su vivienda

la renta con este fin me dirigí

imanol landa solicitándole la colaboración de los ayuntamientos donde alokabide tiene viviendas para poner en marcha un protocolo de actuación preventivo

y que cuando no puedan evitarse provea alternativas para las personas y familias en riesgo de exclusión social tengo que agradecer

el pasado diecinueve de enero la comisión ejecutiva de eudel aprobó el protocolo

el mecanismo es muy sencillo se activa cuando alokabide detecta una situación de riesgo entonces debe ponerse en contacto con el alcalde correspondiente para comunicar el caso y que

para tratar de buscar juntos una salida adaptada a las circunstancias de los afectados y como queremos actuar con la mayor transparencia

alokabide y el inquilino previo consentimiento expreso de este entren en contacto con las asociaciones y colectivos sociales anti desahucio presentes en el municipio

y puedan también participar en la búsqueda de soluciones este es el compromiso de mi departamento y esta va a ser la pauta de actuación

no hay varitas mágicas pero creo de verdad que merece la pena
intentarlo muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

gracias señora presidenta buenos días señor lehendakari por qué no fue usted a la conferencia de presidentes

señor alonso no fui a la conferencia de presidentes por respeto a mí como representante institucional lehendakari de todos los vascos y vascas por respeto a lo decidido por los vascos y vascas en el referéndum en el año setenta y nueve

por su incumplimiento y por la llamada de atención necesaria al incumplimiento por parte del presidente señor rajoy

a las cuestiones de estado que le planteé por esa razón por respeto y por dignidad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna alonso jauna zurea da hitza

voy a hacer algo de oposición poco pero alguien tiene que hacerlo también aquí esta mañana y dice usted que no fue por respeto y es un argumento que yo ciertamente no esperaba usted me ha sorprendido pero claro uno se puede preguntar entonces es que cuando el lehendakari ibarretxe

iba a la conferencia de presidentes a qué faltaba al respeto faltaba al respeto al referéndum del estatuto de autonomía tiene usted que reconocer que su argumento no se sostiene

que no quiere usted participar en nada que tenga que ver con españa o que se pueda considerar que nos hace participar en ese ámbito

su colega la presidenta de navarra que sí que estuvo en la reunión en la conferencia de presidentes el que no estaba

era usted sin embargo ahí se hablaba de asuntos y de temas que son de interés para todos y que implican una necesidad de cooperación y de los que también yo creo que usted y su gobierno tienen mucho que aprender porque ahí se estaba hablando

tiene usted un fracaso en la política de educación que llevó en los últimos cuatro años y sigue con el mismo equipo podía haber aprendido algo o por lo menos escuchar qué es lo que están haciendo bien en otras comunidades que les sale mejor el informe pisa o en empleo usted tiene una tasa de actividad menor que los demás

pero nos acaba de adelantar la rioja y nos seguirán adelantando los demás porque crecemos

a un ritmo mucho menor que el resto de españa por tanto también ahí usted tenía algo que aprender

en materia de política social donde siempre dicen que están en condiciones de dar lecciones a todos los demás y especialmente si usted está en condiciones de dar lecciones a los demás no se puede ser tan egoísta de no ir allí a hacer la aportación para que el resto de la gente del territorio común pudiera

en el punto del orden del día que hablaba de financiación de los territorios de régimen común se fuera a tomar un café porque el vasco es bilateral y nosotros tenemos una relación

de esa actitud completamente incomprensible de no participar y de no ir a las reuniones es que la silla de euskadi estaba vacía no estaba

porque dejó usted la defensa de los intereses de los vascos exclusivamente en manos del gobierno de españa usted no estaba nosotros no estábamos quizás porque su posición tenía que ser la más nacionalista o quería hacer usted exactamente lo mismo

porque por ese camino quizás no nos vaya ir a todos

nuestra silla quedó entonces vacía y nosotros quedamos sin representación y yo creo que ese día usted hizo dejación de sus responsabilidades

sus consejeros seguirán yendo a las conferencias sectoriales y participando el lehendakari también tendría que ir porque es el primero del gobierno entiendo que vamos a participar en los foros y comisiones que han nacido también

de esa conferencia incluso yo quiero creerle cuando viene aquí dice que su prioridad va a ser el crecimiento económico la creación de empleo dar la vuelta a las políticas que han fracasado los últimos cuatro años yo le quiero creer pero tiene que usted iniciar un camino distinto de cooperación y tiene que usted dar gestos

de los que son de su partido de los que se sienten nacionalistas y por tanto estar siempre
donde haya algo que defender de nuestros intereses gracias eskerrik asko alonso jauna lehendakari jauna zurea da hitza

señor alonso respetando lo que haya podido ser su intervención me ha dado la impresión de que ha empezado usted la intervención aquí en el atril con un tono de chiste jocoso y para mí esta es una cuestión muy seria

respeto y dignidad mire dejación dejación que ha utilizado usted en la pregunta

no ha dado respuesta a los asuntos de estado que como máximo representante de los intereses de los vascos de todos los vascos señor alonso

le he planteado en cinco reuniones mantenidas en la legislatura pasada la última el quince de septiembre del año dos mil quince y cuya documentación

la decisión de no participar en la conferencia ha servido como recordatorio y como llamada de atención un recordatorio de la singularidad del autogobierno vasco y una llamada de atención sobre las relaciones de carácter bilateral ha sido una decisión meditada y comunicada al presidente mariano rajoy en una extensa carta que le envié

el dieciséis de diciembre un mes antes de la conferencia

hasta hoy lo paradójico es que el orden del día además del tema de la financiación autonómica que no nos corresponde señor alonso y fíjese usted que podía haber salido a tomar un café mire qué seriedad

y elude la cuestión nuclear el problema del modelo territorial del estado es incomprensible en una conferencia de presidentes eludir el problema del modelo de estado cuando se plantean abordar temas que ya tienen su cauce

incluso temas que tienen que ser derivados a las cortes generales del estado y eso lo tenemos que decir los presidentes de las comunidades autónomas suplantando el papel de las cortes legislativas

he manifestado mi respeto a la conferencia de presidentes señor alonso y me pregunta o ha hecho usted

en las reuniones de los grupos de trabajo por supuesto que sí porque la respuesta ya está en la carta que le ofrecí al señor el dieciséis de diciembre en esta misma carta yo hacía mención a esa cuestión euskadi ha participado en los foros de relación sectorial y lo va a seguir haciendo

euskadi ha demostrado que la relación bilateral es positiva para el autogobierno y el bienestar de la ciudadanía preservarla es nuestra responsabilidad y la vamos a seguir cumpliendo mi responsabilidad es mirar en todo caso al futuro

la relación bilateral reactivar el diálogo y esto es lo que también le planteo al señor rajoy en la carta del dieciséis de diciembre y hasta hoy son cuestiones que cuentan con el respaldo expreso de este parlamento

actualización y profundización del autogobierno liquidación del cupo renovación de la ley quinquenal actualización del concierto económico respuesta a la crisis económica política

hau ere esan zenuen tenemos que considerar que las negociaciones sobre este tratado incluyen ámbitos que recaen además

en ámbitos mucho más locales y regionales y que las administraciones competentes y los parlamentos correspondientes deberán hablar bigarren galdera

eta hau ere esan zenuen además el gobierno vasco en ejercicio de la transparencia que reclama va a impulsar la celebración de sesiones informativas con todos y cada uno de los agentes de la sociedad civil de este país

zergatik otro ámbito que nos preocupa y mucho es la pequeña y mediana empresa teniendo en cuenta que hablamos de más de un noventa y nueve por ciento del tejido empresarial en pequeña y mediana empresa y teniendo en cuenta que según los datos que tengo yo

solo el cero coma ochenta y cinco por ciento de las pymes vascas exportan a canadá no les parece que es un poco ingenuo pensar que el acuerdo tiene más de oportunidad que de amenaza

y no al revés y si piensan que es una oportunidad en qué se basan hay algún estudio que lo indique o estamos hablando de pura fe

si bien canadá ha sido históricamente un paraíso natural su caída en desgracia coincide con la puesta en marcha de otro tratado de este tipo

desde entonces canadá ha sido incapaz aprobar normas de protección ambiental porque inmediatamente provocaba demandas en tribunales de inversión

un perverso efecto que se conoce como inhibición regulatoria ya que el miedo a las demandas en los tribunales de justicia privada ha provocado que no se pueda regular

canadá es hoy el país del mundo con mayor tasa de deforestación y pierde de media dos millónes de hectáreas de bosque para ponerlo en contexto dos millónes de hectárea es euskal herria entera cada año y por poner un solo ejemplo de lo que significan los tribunales de impresión les contaré para terminar el caso de long pine que puede ilustrar muy bien la que se nos viene encima

sector hidrocarburos con licencias de fracking en quebec quebec por precaución pone una moratoria al fracking

dice cómo que prohibir el fracking yo os demando

como empresa canadiense tiene que ir a la justicia ordinaria a reclamar pero a través del tratado de libre comercio encuentra una vía más efectiva por dónde

en estados unidos y ahora ya como empresa transnacional

resultado pone una demanda de lucro cesante sin invertir un solo dólar por valor de doscientos cincuenta millónes de euros qué les parece el cuento qué les parece si les digo que cualquier empresa americana podría a través de sus filiales de canadá hacer lo mismo aquí

agradecerle el tono de su intervención a pesar de que como se imagina no coincidamos ni mucho menos en el fondo de la cuestión que hoy en nombre de su grupo parlamentario interpela al gobierno

desea conocer la posición del lehendakari y del gobierno sobre el acuerdo del libre comercio ceta suscrito por la unión europea y canadá

lo que trataré de hacer para empezar a hablar

sobre la propia realidad de nuestro país antes de perdernos en grandilocuentes divagaciones sobre geopolítica y estrategias globales es pequeño como es euskadi debe ser por fuerza un país abierto al exterior

son necesariamente más abiertas porque son capaces de producir menos cosas y se especializan en un ramillete de productos que les permite financiar un amplio conjunto de necesidades de importación en términos de peso de sus intercambios en pib nuestras exportaciones suponen el sesenta y cinco por ciento

el treinta y cinco y nos permiten exportar al exterior el treinta por ciento y por parte de las compras del resto del estado suponen algo más del cuarenta y dos por ciento del pib y el veintisiete por ciento del resto del mundo

de la especialización en el hierro y la prohibición de exportar mineral según el fuero

a la acumulación de la industrialización del siglo diecinueve hasta la economía

pero lo cierto es que la necesidad de exportación ha sido permanente y que los periodos recientes con un desempeño más brillante de la económica vasca han ido

un proceso que precisamente ha volcado buena parte de los intercambios desde el resto del estado a los mercados internacionales digo esto porque siguiendo los debates habidos en esta cámara a uno le queda la impresión de que no siempre se comparte

se hacen con garantías de promover el propio modelo de desarrollo por más que siempre también se exijan esfuerzos de adaptación en la pasada legislatura se dijo aquí que el nafta ha ocasionado el empobrecimiento masivo

en estados unidos parece que el libre comercio no puede ser peor no es ya que

las evidentes ganancias de comercio y la especialización a veces puedan suponer una tendencia a la igualación a la igualación de reproducción de los factores

y que la apertura al exterior es la única forma para que euskadi esté en el mundo

que da a entender que el libre comercio es una idea impulsada por unos empresarios desaprensivos y malvados que manipulan a unos políticos estúpidos que no dudan

los acuerdos comerciales de integración han sido para nosotros una fuente de progreso económico y los seguirán siendo siempre que se hagan en condiciones suficientes algo que es más fácil de conseguir cuando las economías que se integran no tienen grandes divergencias en sus niveles de desarrollo bien una vez sentado esto he de decir que el acuerdo económico y comercial global más conocido también como comprehensive economic and trade agreement ceta

que se traduce en la eliminación de los derechos de aduanas especialmente de los productos industriales apertura del mercado de servicios acceso a los contratos públicos

y todo ello respetando las normas europeas de seguridad alimentaria los derechos de trabajo y garantizando el medio ambiente y la salud de los consumidores

o sí se prefiere una mayor integración entre dos economías avanzadas de la que cabe esperar ganancias económicas y que cuenta con garantías para los estándares europeos de seguridad y calidad no obstante no vamos a echar las campanas al vuelo y a glosar

que se alcanzaría nada menos que un veintitrés por ciento según se dice no nos importa admitir que tanto esas grandes cifras como las grandilocuentes acusaciones son más fáciles de denunciar

el acuerdo por fuerza va a ser limitado el impacto va a ser limitado en euskadi porque como todos sabemos las relaciones de euskadi con canadá son realmente pequeñas

de las exportaciones vascas en el dos mil catorce tuvieron como destino canadá

millónes de euros lo que le convierte en el país treinta y seis del ranking por destinos

representan el cero coma seis por ciento apenas noventa y nueve millónes treinta y uno en la posición del ranking

la apertura representa un territorio de oportunidad porque sí bien se trata de un país mediano con una población de treinta y cinco millónes de habitantes

y figura a la cabeza de la productividad mundial en muchas actividades euskadi tiene mucho que ganar acercándose a canadá porque aunque es verdad que es un pequeño mercado

tampoco hay que olvidar que toda norteamérica representa todavía hoy y esperemos que también en el futuro

y que ha sido un modelo a la hora de afrontar la crisis desplegará un ambicioso programa

para abordar operaciones comerciales en el conjunto del norte de américa es bien conocido que el acuerdo se vio puesto en entredicho en algunos aspectos tal como lo ha comentado el señor otero por la posición de bélgica a instancias de la región de valonia y también por las posiciones reticentes de algunos otros países

además de cuestiones agrícolas un tema central ha sido la no aceptación de los mecanismos

pero esas dudas señor otero como bien sabe fueron disipadas para propiciar la culminación exitosa del acuerdo y finalmente el mismo parlamento de valonia lo aprobó por abrumadora mayoría tampoco es ningún secreto que el acuerdo ha nacido

que ha contado con una leyenda negra basada supuestamente en el oscurantismo

de las relaciones económicas que desplazaría a la regulación estatal ahora se presenta desplazar las mismas acusaciones al ceta motejándolo de caballo de troya de ttip cuando en la realidad no hay soporte alguno en nuestra opinión

a la vista de los textos aprobados seguramente la unión europea ha aprendido muchas lecciones acerca de la transparencia y la responsabilidad durante todos estos procesos de negociación y las críticas de que han sido objeto estas instituciones europeas son instancias

que nada tienen que ver con las antiguas negociaciones multilaterales de la organización mundial de comercio y sus rondas como la última fracasada ronda

el marco de liberalización que insistía anteriormente

yo por mi parte no tengo ningún empacho en reconocer que los movimientos de crítica a los acuerdos comerciales han hecho una aportación positiva en el sentido de avanzar hacia una mayor transparencia y control de la ciudadanía es más

como un modelo para en su caso retomar las negociaciones con estados unidos que representan mucha más dificultades

de las garantías también en ese sentido creemos que considera consideramos que representa una aportación

no sé si esto va a ser un diálogo de besugos o de sordos o de lo que sea

sobre las cosas que ha dicho nos preocupa

más que en el comercio justo entendemos que es un concepto bastante más interesante

que se trata de liberar para las empresas el acceso a los contratos públicos

evidentemente contratos públicos no los hay solamente en canadá también los hay aquí y un acuerdo de libre comercio precisamente

liberar esos contratos y a menudo esos servicios públicos

acerca de las dudas que han quedado disipadas tras el conflicto de valonia primero creo que le da valor al propio conflicto

despejadas y hay una duda que es fundamental y es que han realizado un documento interpretativo de las mil seiscientos páginas de las que consta el acuerdo que solamente doce páginas

pero aquí tenemos un problema nos encontramos con la convención de viena sobre el derecho de los tratados en los que explica que la jerarquía es

ni una coma y quién va a resolver estos litigios quién se ha dicho que va a resolver estos litigios el sistema arbitral una vez más

privado porque sigue siendo privado a pesar de los cambios que se han hecho

sobre los estándares

que no van a cambiar igual tal vez la mejor respuesta que puedo darle y voy a terminar mi intervención con esto es esta

igual no se ve del todo lo tengo que explicar un poco esto es canadá

hasta hace poco ahora es el territorio donde se está desarrollando el mayor

handiena vale en canadá este es uno de los factores principales por los que

el bosque se está perdiendo y se ha convertido en una de las primeras o sea el mayor deforestador mundial por decirlo aquí las arenas bituminosas

incluso antes de que se empezara a negociar el acuerdo

en dos mil nueve la unión europea aprobó reformar la directiva de calidad de combustibles con el objetivo de lograr reducir en un seis por ciento las emisiones asociadas

tienen el ciclo de vida completo un veintitrés por ciento más de emisiones por lo que se sabía

con el objetivo de cumplir los compromisos de emisiones sobre el cambio climático estaba claro que tenía que prohibir la importación de arenas bituminosas de canadá qué pasó que las grandes compañías que estaban explotando estas arenas bituminosas empezaron a ejercer presión cuál era

porque en el dos mil nueve se empezó a negociar el ceta el acuerdo de libre comercio de europa canadá el mejor punto de presión

fue presionar para que la directiva no se pusiera en marcha

objetos golosos en la importación yo lo que quiero decir con esto es que la inhibición regulatoria que viene asociada a los tratados de libre comercio está haciendo efecto ya

me da la sensación de que en su planteamiento estaba poniendo

a mí me cuesta pensar que un acuerdo comercial con un país desarrollado como canadá

un poco las causas de los males que a mí desde luego sinceramente en este momento se me escapan desde luego yo creo que en su intervención y

está plagada de ciertos temores utópicos que están al uso pero que yo creo que efectivamente hay que ponderar a la hora de analizar una cuestión de estas como es

esto es lo que he intentado yo trasmitirle y cuál es la posiciones moderada pensando desde un punto de vista objetivo en lo que pueden suponer unas relaciones comerciales entre euskadi canadá dos ámbitos desde luego

respeten todo lo que tengan que respetar en materia de empleo en materia medioambiental

etcétera mire señor otero hoy precisamente

levanta el puño y amenaza a medio mundo con medidas proteccionistas

del partido comunista se rige en defensor del libre cambio sí señor otero el mundo está lleno desde luego

sorprendentes pero por lo que veo en algunas posiciones como las suyas

el mundo entero sinceramente no está preocupado por la diversión de comercial y al menos de la unión europea y canadá yo creo que esa no es la preocupación de todas formas si quiere seguir hablando de esta cuestión lo podemos hacer en esta cámara porque en esta cámara

relevantes para ello está preocupado por la sombra del proteccionismo europa y el mundo hoy

que se pueden desarrollar por el acuerdo que usted plantea los catastróficos efectos pueden venir del gobierno de los estados unidos imponiendo

que no solo destrozarían las cadenas de valor en los que nosotros estamos también integrados sino que podrían desatar una oleada de guerras comerciales de las que ni siquiera se vería libre la unión europea

y no me refiero a ser un tercer afectado sino incluso a sufrir a las consecuencias del proteccionismo de una forma directa como sabe el asesor especial en materia

ya ha lanzado acusaciones directas hacia el euro dirigidas a la competitividad alemana enmascarada en los beneficios

del que haríamos bien en tomar nota hoy el desafío mayor para nuestra estabilidad económica en nuestro nivel de vida

es que ese acuerdo salte por los aires hoy el ceta representa una oportunidad también para mitigar el impacto de la incierta política comercial americana

de algunos de sus efectos haríamos bien en no perder el rumbo en lo que siempre ha sido

eskerrik asko mahaiburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok el pasado nueve de enero comunicaba usted a través de los medios de comunicación que pretende viajar a roma para visitar a la comunidad de san egidio

el pasado doce de enero viajó finalmente a roma con una delegación del gobierno vasco formada por la secretaria de acción exterior

ese mismo día registramos la interpelación que viene a responder hoy y curiosamente ayer mientras estábamos en pleno ordinario ha tenido usted a bien responder en diferido a mi pregunta

que entiendo que no supone un cambio significativo en sus planes pero en todo caso gracias por la respuesta no sé si querrá usted igualmente utilizar estos diez minutos para comentarme en concreto

en cualquier caso creo que es importante que traslademos algunas cosas atendiendo a lo que presentaron ayer

la primera cuestión que queremos trasladar es que entendemos que el hecho de que usted acuda personalmente con su equipo a una cuestión como esta demuestra la importancia que le dan al proyecto pero si soy honesta me a pena

de las personas migrantes y refugiadas entiendo pero tal vez estoy equivocada que si se conforma un grupo de trabajo para poder enfocar la acogida desde una perspectiva integral y consensuada

entendemos que también hubiera sido positivo contar con la representación de la sociedad civil y o de organizaciones expertas en la acogida en euskadi en la comitiva que le ha acompañado a roma pero sobre todo creemos que cuanto menos es curiosa salir a prensa un día antes de que usted rinda cuentas al parlamento sobre este tema

en cualquier caso reiteramos que nuestra valoración es muy positiva en relación a las acciones que se plantean señor lehendakari la segunda es que en nuestra opinión también este tipo de propuestas deben trabajarse con cautela y con una mirada integral

de la iglesia porque por qué no compartir también experiencias con otros actores como los ayuntamientos del cambio que hace ya un año adelantaron en solidaridad y buen hacer por qué no hablar con la ciudadanía vasca organizada

es y ha sido históricamente un ejemplo de solidaridad y coherencia

las decisiones que no cuentan en algo tan grave con muchas visiones para aportar

en elkarrekin podemos tenemos la intención de trabajar intensamente en este ámbito con el ánimo sincero de lograr acuerdos que mejoren la situación de las personas refugiadas en este sentido repito la lectura que hacemos del viaje y de la decisión que espero que nos describa en detalle a continuación pero nos preocupa que quede en un titular porque si en un plazo de una semana puede poner usted en marcha un corredor humanitario y su compromiso es tan de peso por qué no se ha hecho antes

meses las personas refugiadas nos esperan desde hace mucho tiempo san egidio

este corredor humanitario no quiero decir que su gobierno tenga que paralizarse solo que la impresión que creemos que puede quedar a buena parte de la ciudadanía pero sobre todo al movimiento de solidaridad vasco

cuanto menos sorprende dadas las reiteradas manifestaciones que ha hecho este gobierno de la incapacidad de acción en relación a la postura del gobierno del estado

podría definir en lo concreto qué significa la parte de la propuesta presentada

el sistema ordinario es cierto que no funciona bien ya presentaba debilidades estructurales que la coyuntura actual ha agudizado o profundizado pero la crisis actual no es la causa de las debilidades del sistema créame que se lo digo por experiencia

se realizará mientras dure esta situación excepcional las guerras los desplazamientos la trata de personas las persecuciones por motivos de orientación sexual por motivos políticos etcétera lamentablemente no son excepcionales son realidades que han sucedido que suceden y que sucederán

la necesidad de refugio no es algo coyuntural no es un hecho puntual es una necesidad permanente de miles de personas para salvar sus vidas por qué una política temporal es cierto es necesario complementar y reforzar el actual sistema pero por qué no avanzar hacia un sistema ordinario de acogida con más capacidad

tenemos capacidad de hacer esto para transformar podremos hacerlo con el aporte de los grupos de este parlamento transformar que implica poner para nosotras cuatro patas a esta mesa

y realizar una mejora efectiva en las condiciones y recursos de la acogida para quienes ya están aquí y para quienes tienen que venir pero por último también trabajar con la participación ciudadana para mejorar la convivencia y canalizar la solidaridad que ha demostrado una sociedad que está por encima de las instituciones que las representa

señora guanche he recogido con interés y lo he anotado en relación a los que puedan ser sus interrogantes a participar o a compartir con el intergrupo parlamentario

la intencionalidad de lo que pueda ser nuestra actuación también he recogido también la pregunta con respecto a la concreción sobre el sistema de refuerzo complementario

la duda sobre la excepcionalidad pero en todo caso señora guanche me va a permitir comenzar ofreciendo algunos datos de contexto sobre los antecedentes y la situación actual

el año dos mil quince emergió una grave crisis humanitaria en el mediterráneo con cientos de miles de personas huyendo de la guerra y en este contexto el gobierno español que es el competente

mediante reubicaciones reubicaciones que son personas solicitantes de asilo

y también mediante reasentamientos reasentamientos que son

de fuera de la unión europea principalmente de turquía y del líbano en aquel momento el gobierno vasco

de inmediato se establecieron tres marcos de trabajo y coordinación el ámbito interdepartamental

y el ámbito social entre las administraciones públicas y las entidades sociales que trabajan en relación

se crearon además grupos de trabajo territorial de perfil técnico en este contexto el gobierno vasco expresó su disposición a recibir a corto plazo al menos a mil personas a finales del año dos mil dieciséis las personas acogidas por españa mediante reubicaciones o reasentamientos han sido un total de novecientos ochenta novecientos ochenta de diecisiete mil doscientos veintiocho previstas

en las que han sido acogidas quinientos setenta personas sin embargo de las quinientos setenta personas solo cuarenta y seis personas procedían de reubicaciones

en el cupo al gobierno del estado español el resto de plazas en euskadi han sido ocupadas por personas de distintos lugares del mundo que han llegado a territorio del estado español

hemos hecho más en dos mil dieciséis a través de la agencia vasca de cooperación hemos financiado cuatro intervenciones de ayuda de emergencia para tratar de paliar la grave situación que están atravesando las personas refugiadas en los países limítrofes donde quedan atrapadas no es por lo tanto una cuestión de excepcionalidad señora guanche hemos invertido setecientos setenta mil euros en colaboración con acnur

con emigrados sin fronteras en actuaciones desarrolladas en siria en irak en jordania

este es el contexto y como usted sabe señora guanche en el inicio de la presente legislatura hemos decidido situar la coordinación de la respuesta a la crisis de las personas refugiadas

esta decisión responde a la determinación de reforzar el enfoque de derechos humanos en el conjunto de la acción del gobierno desde una perspectiva global e interdepartamental

en segundo lugar creo relevante poder explicar la génesis y el sentido de la visita oficial a roma que la delegación del gobierno vasco que encabecé realizó entre el once y el trece

en la edición del pasado año este galardón fue entregado a tres organizaciones comprometidas en la solidaridad con las personas refugiadas

salvamento marítimo humanitario y la comunidad de san egidio recibieron este premio

pero por razones de lo que era el tiempo de permanencia hasta finales de enero según se nos comentó no era posible abordar este viaje hasta quíos

a la creación de los corredores humanitarios y dado que desde el verano de dos mil dieciséis el gobierno vasco venía haciendo un seguimiento de esta propuesta

la experiencia de gestión de estos corredores para la acogida de personas refugiadas

así como también los programas de integración social de estas personas de este modo se gestó la visita y la agenda de la visita a roma con este objetivo central y de la mano de la comunidad de san egidio

eta boluntarioak eta gizarte zibil antolatua conocido el contexto y los objetivos del gobierno vasco señora guanche he querido responder de forma específica a su interpelación

así hemos definido dos propuestas concretas para mejorar la capacidad de acogida

la primera propone en relación a lo que es su planteamiento con el sistema de refuerzo complementario lo que propone es ampliar el sistema ordinario de acogida

de refuerzo complementario en el que las comunidades autónomas juguemos un papel directo en la canalización de los procesos de acogida algo que ahora no ocurre según el sistema ordinario

construida de abajo hacia arriba mediante la colaboración de ayuntamientos diputaciones comunidades autónomas y entidades sociales con el gobierno español es decir que no sea el gobierno español quien diga cuántas personas refugiadas

acogerse en la comunidad autónoma del país vasco sino que seamos nosotros las comunidades autónomas y particularmente nosotros quienes planteemos cuántas deseamos en función

se centra en la puesta en marcha de una experiencia piloto para desarrollar la vía de los corredores humanitarios en euskadi la comunidad

además con las comunidades ecuménicas y también el segundo corredor humanitario con la conferencia episcopal italiana por eso la razón también

su soporte legal se encuentra en el artículo veinticinco del reglamento europeo de visados que contempla la posibilidad de extender visados con limitación territorial

que también nos preocupa esta opción permite trasladar de manera legal y segura a personas solicitantes de asilo especialmente si se encuentran en situación de vulnerabilidad

primero el pasado veinticinco de enero procedimos a entregar directamente al gobierno español la doble propuesta ese mismo día además

convocada por la secretaría general de emigración e inmigración del gobierno español segundo el veintisiete de enero organizamos aquí en gasteiz una reunión interdepartamental para coordinar los trabajos necesarios en relación a las dos propuestas presentadas tercero hemos presentado ambas iniciativas a representantes de las tres diputaciones a eudel los ayuntamientos de las tres capitales así como a las organizaciones sociales que trabajan en los ámbitos de acogida e integración de personas refugiadas estamos trabajando

estamos trabajando aquí en euskadi con cear euskadi con cáritas diocesana estamos trabajando también

estamos trabajando con cruz roja y cuarto hemos mantenido un encuentro de trabajo con los obispos vascos por lo que decía antes de la participación de la conferencia episcopal italiana en italia y la posibilidad de la participación de la conferencia episcopal española aquí en el estado español y en el proyecto de los corredores humanitarios centrado por lo tanto en analizar las posibilidades de colaboración en la respuesta

en la actualidad el gobierno vasco trabaja en la gestión de estas dos propuestas en cuatro ámbitos de cooperación gobierno español e instituciones europeas instituciones forales y locales entidades homologadas que gestionan los programas de acogida del gobierno español

compartimos la estrategia y trabajamos juntos y seguiremos trabajando juntos señora guanche eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna guanche andrea zurea da hitza

conozco de primera mano y he seguido en primera línea lo que se ha hecho y reconozco que en ese quehacer ha habido cosas positivas y ha habido cosas para mejorar y luego hay camino por recorrer y desde luego he insistido a lo largo de mi intervención que en esto no venimos a pelear sino a buscar maneras de trabajar

insisto también en que la valoración del planteamiento de trabajo es positiva pero nos preocupa

de las personas refugiadas como una crisis puntual porque entendemos que esto no es algo temporal y entendemos que los dispositivos y los planteamientos de trabajo que se marquen en esta tienen que tener un carácter estructural y sobre todo que incida en la buena coordinación entre las administraciones para no correr el riesgo de que las personas se nos pierdan por el camino estaremos atentas y dispuestas a seguir trabajando

también tener margen para aportar entendemos que en euskadi articular esa estrategia de apoyo es urgente

una estructura temporal por otro lado ha hablado usted en su intervención de la colaboración con el estado y entonces a mí me vuelve la preocupación porque

a cumplir de repente pero bueno iremos viendo

su trabajo pero sí que nos preocupa que al hacer esto no haya contado con la respuesta de la sociedad civil organizada vasca

y creo que es interesante que este gobierno les tenga en cuenta también para encontrar estrategias de trabajo entiendo que la población es un agente fundamental al que darle cabida en cualquiera de los casos eskerrik asko

eskerrik asko legelbiltzaburu andrea señora guanche reiterando

una respuesta de manera puntual a la crisis también antes le he explicado cuáles son las actuaciones que más allá de las iniciativas estas concretas que hemos pretendido poner en marcha estamos abordando desde la agencia vasca de cooperación al desarrollo con carácter estructural también en relación a esta cuestión y evidentemente queda camino por recorrer

afirmar por ejemplo que algo está fallando en la respuesta que europa ofrece a la crisis

también lo es señalar que es necesario promover una respuesta que ofrezca mejores soluciones en este sentido el día ocho de enero del año pasado del año pasado

me dirigí mostrando nuestra disposición a colaborar en la solución a este grave problema tomando como base razones humanitarias de responsabilidad y legalidad

consecuencias y soluciones asociadas a esta cuestión

es que las decisiones que deben adoptarse corresponden a diversas instancias como usted ha mencionado de poder sectorial o territorial con capacidad de decisión parcial pero con un enorme poder de incidencia global sobre el proceso de soluciones

requiere reconocer que una colaboración multilateral es indispensable por eso también nuestra disposición es necesario poner en común una prioridad ética capaz de anteponer la causa del bien común de la solidaridad

en europa la solidaridad debe ser nuestra primera patria nuestra prioridad

y prudencia por supuesto es imprescindible participar de un clima de confluencia de voluntades de confianza y de cooperación defendemos que cada institución pueda realizar su contribución para la creación de este contexto por tratarse de un compromiso

y los derechos humanos con nuestra iniciativa tratamos de predicar con el ejemplo en esta línea de acción es cierto que hasta principios del año dos mil quince

con un sistema ordinario de acogida también es cierto que a partir del año dos mil quince se produce un desbordamiento de la situación europa debe hacer

una situación extraordinaria de cientos de miles de personas que huyen de la guerra y en el caso español en este nuevo contexto se ha seguido utilizando el mismo sistema ordinario para hacer frente a una situación extraordinaria

como por su alcance la segunda clave para mejorar la respuesta a la crisis humanitaria es complementar mientras dure esta situación excepcional el sistema ordinario con un sistema de refuerzo complementario no quiere decir que esto muera ahí y también complementarlo con otras vías

humanitarios el criterio es articular una infraestructura de respuesta construida de abajo hacia arriba mediante la colaboración ayuntamientos diputaciones comunidades autónomas y entidades sociales

nuestro ámbito competencial nos corresponde la colaboración y la facilitación el objetivo operativo inmediato es comunicar al gobierno español el número de personas que está en disposición de acoger en los próximos dos años para poder responder como mínimo a los compromisos asumidos de reasentamiento y de reubicación y señora guanche termino reiterando que en este tema más que en ningún otro es necesario dejar de lado

debemos crear un espacio de colaboración real porque sin colaboración no hay solución y en este sentido

se pone a disposición del intergrupo creado en este parlamento para ampliar ese ámbito de colaboración también hacia esta institución que es el parlamento y sus grupos parlamentarios

concluida la larga investigación judicial ha formulado acusación

que entonces dirigía el lehendakari ibarretxe y del que era consejero de sanidad el señor inclán

rafael cerdán el exjefe de calidad del hospital de cruces señor margüello

se pusieron de acuerdo para cometer irregularidades en la contratación

en concreto la fiscalía les acusa de los delitos de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación fraudes ilegales contra la administración y un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos la fiscalía ha solicitado penas de prisión que suman cuarenta años de cárcel once años de prisión para tres de los acusados y seis años y medio para una de las cuartas acusadas

reclamado que abonen conjunta y solidariamente una indemnización

en la que se cifra el perjuicio económico ocasionado por el contrario hemos tenido conocimiento que el gobierno vasco personado como acusación particular no ha solicitado pena de prisión para los acusados

presentando escrito de conclusiones pero ha renunciado a formular escrito de acusación y ejercitando exclusivamente la acción

el gobierno vasco para sorpresa de todos ha mantenido un criterio

no ha solicitado penas de prisión todo ello a pesar de estar personado en la causa eso sí como acusación particular y también hay que decirlo que se personó

el gobierno vasco por lo tanto ha renunciado a solicitar penas de prisión señor lehendakari para los acusados en uno de los casos de corrupción más graves que

usted señor lehendakari tendrá que explicarnos hoy por eso este grupo ha formulado esta interpelación por qué su gobierno el gobierno que usted preside ha renunciado a presentar escrito de acusación y ejercitar exclusivamente la acción civil este caso como todos ustedes recordarán

que realizó un trabajo exhaustivo y riguroso

intentos de algunos de desacreditarla en todo momento nueve meses de trabajo cuarenta y nueve comparecencias y señorías para muestra un botón

por todos ellos ostentan ahora responsabilidades en su gobierno señor lehendakari como es el señor

consejero de sanidad y la señora múgica directora de osakidetza

una sesión de la comisión de sanidad también están el señor elorriaga y también está el señor una declaración leída por el señor inclán y suscrita por diecisiete ex altos cargos alguno todavía cargos del departamento de sanidad

pero es que en esas declaraciones se negaban las irregularidades y se calificaban

de corrupción que se vertían las conclusiones de la comisión de investigación están ahí están publicadas en el boletín oficial

fueron aprobadas en esta cámara con el voto en contra del partido

el partido nacionalista vasco vuelve a votar en contra ellos sabrán por qué

se habla cómo estas irregularidades se dieron en beneficio de unas empresas

cómo a pesar de las continuas advertencias de legalidad se reiteraban estas actuaciones en el tiempo

reiterada que limitaban la concurrencia cómo la característica de todas estas actuaciones irregulares coincidía el mismo número de personas el mismo grupo de personas que llevaban directamente las negociaciones con la administración cómo se creó una empresa ad hoc gestión de servicios sanitarios

único cliente era el departamento de sanidad

prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido desde luego estas conclusiones concluyeron que resultaba cuanto menos sospechoso el comportamiento de la administración al adoptar la decisión de derivar una empresa de reciente

que se había ocasionado un perjuicio económico para las arcas públicas que hoy ya sabemos que es de seis coma ocho millónes de euros

de forma conjunta y solidario a los acusados y también que

era difícil de creer que se hubieran realizado sin el conocimiento de los responsables del entonces equipo de sanidad

gai batean eta korrupzio gai batean alde batean ipintzen dela el gobierno vasco se vuelve a poner de lado en un claro caso de corrupción con un importante perjuicio económico cifrado en un seis coma ocho millónes de euros

que usted preside señor lehendakari vuelve a renunciar a ejercer su responsabilidad en un caso de enorme gravedad nuevamente este gobierno

para proteger a los acusados en el caso margüello berriro kasu honetan irizpide partidistak kontuan hartzen dira akusatuak babesteko

hasta cuarenta años ustedes cero penas

una vez más señor lehendakari vemos que cuando este gobierno el gobierno que usted preside tiene que defender los intereses de todos los vascos y todas las vascas lesionados por personas vinculadas al partido nacionalista vasco por amañar contratos públicos en beneficio propio se inhibe parece que no va con el

en el ejercicio de su responsabilidad que no ha estado a la altura de las circunstancias no valen excusas señor lehendakari ahora no me puede decir aquello que me dijo hace unos meses cuando le pregunté sobre esta cuestión a propósito de que conocido el auto de instrucción en el que ya se decía que había indicios

con las manifestaciones y las conclusiones de la comisión de investigación por eso señor lehendakari le digo que no valen excusas

no han ejercido su responsabilidad ustedes no están defendiendo los intereses de todos los vascos en este asunto ahora no me podrá decir

como me dijo entonces que no existe auto acusatorio ahora existe auto acusatorio señor lehendakari ustedes

de acusación y a solicitar penas de prisión usted hoy tendrá que explicar aquí cual ha sido el criterio mejor dicho cual ha sido el propósito que ha llevado a su gobierno a mantener una discrepancia radical con el criterio de la fiscalía es que choca mucho lehendakari

ese criterio tan dispar entre la fiscalía y el gobierno que usted preside que está presentado como acusación particular

que ustedes no decidieron presentarse como acusación particular

pero usted tendrá que explicarnos hoy aquí la discrepancia entre el criterio de la fiscalía que ha solicitado penas de prisión de hasta cuarenta años y el criterio de su gobierno que usted preside

horregatik hau guztia lehenbailehen argitzea da gure nahia el tema que hoy trae a este parlamento para el gobierno vasco es de la máxima seriedad señora garrido este gobierno es el primer interesado en que esta cuestión se juzgue señora garrido que todavía no ha ocurrido y se esclarezca cuanto antes

de instrucción número tres de bilbao de dictar apertura de juicio oral

dicha apertura al evacuar su último trámite de alegaciones el pasado veintitrés de diciembre ahora discursos aparte corresponde el turno de escuchar a la justicia y esperar el veredicto porque señora garrido nosotros respetamos a la justicia

e independencia y les invitamos desde el máximo respeto a que también ustedes desde esta cámara

institucional el caso fue profusamente debatido en el seno de este parlamento especialmente los años dos mil diez y dos mil once

fueron muchas las personas que acudieron a ofrecer su relato

y como consecuencia del trabajo realizado se elaboró un informe de conclusiones y recomendaciones informe que el departamento de salud ha tomado en consideración desde el gobierno entendemos y asumimos que esta fase ha concluido ya este caso se encuentra actualmente en manos de la justicia

emitir un veredicto y por supuesto el gobierno le corresponderá

y así lo haremos por ello en aras a defender el interés general el ejecutivo se mantiene en el proceso judicial señora garrido

nunca se ha retirado se mantiene como actor civil para poder solicitar el resarcimiento si se demostrara

señora garrido dice usted que el gobierno vasco mantiene la discrepancia con la fiscalía

en que en tanto no haya un veredicto podemos tener una opinión propia sobre todo

como es el caso en el criterio de los servicios jurídicos del gobierno le voy a recordar la existencia de ni más ni menos de nueve procedimientos previos

resueltas todas ellas con anterioridad sin condenas que aunque usted parece no respetar ni tener en cuenta los servicios jurídicos del gobierno entienden que deben estar sobre la mesa a la hora de adoptar una posición conviene aclarar también que mientras el ministerio fiscal corresponde salvaguardar en abstracto el conjunto de la legalidad y perseguir los hechos

al ejecutivo le corresponde la personación en el caso que como le he dicho no se ha retirado y defender los intereses en representación de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas vascas los servicios jurídicos del gobierno han analizado el caso con detenimiento

como actor civil de este modo si el tribunal dictara que ha existido delito penal y que de dicho delito se derivara un perjuicio económico para las arcas públicas

del posible quebranto patrimonial es decir tomará las medidas oportunas para que se

tenga por seguro que actuaremos con la máxima responsabilidad y rigor

en este gobierno no comparto su escenificación probablemente el único objetivo es aprovechar un episodio sucedido hace diez años para tratar de minar la confianza que la sociedad vasca ha demostrado tener en el partido nacionalista vasco que sustenta

y al que se le pretende identificar en tramas según los casos en curso cuando nada de ello existe tal y como se viene demostrando en los procesos judiciales

apostamos por una gestión rigurosa responsable y transparente de hecho ya en su primer debate de investidura celebrado en diciembre del dos mil doce

planteó la necesidad de recuperar el sentido ético de la política y asumió el firme compromiso de adaptar medidas que contribuyan a hacer efectiva

compromiso que se materializó la pasada legislatura con diversas medidas de actuaciones que mantenemos íntegramente en la legislatura actual en el gobierno vasco creemos y apostamos

y por la gestión rigurosa de los recursos públicos con un ejercicio responsable de la función pública precisamente con el objetivo de avanzar en esta línea

la ley uno barra dos mil catorce reguladora del código de conducta y de los conflictos de interés de los cargos públicos ley que fue desarrollada posteriormente en el decreto

sobre obligaciones y derechos del personal cargo público en esta misma línea el gobierno vasco también en la anterior legislatura aprobó el proyecto de ley de transparencia

ciudadana y buen gobierno del sector público vasco que lamentablemente no fue aprobado por esta cámara dicho proyecto tenía por objeto ampliar y reforzar la transparencia y publicidad de la actividad administrativa el buen gobierno

ematea da señora garrido dejemos pues actuar a la justicia y que sea esta quien dictamine si ha habido o no delito penal o no perjuicio económico no adelante usted acontecimientos cuando todavía no corresponde no haga juicios paralelos sin garantías jurídicas

la presunción de inocencia es un derecho que corresponde a todo imputado en un proceso penal hasta que una sentencia firme establezca su condena por tanto

de inocencia insisto no podemos obviar que han sido nueve las causas resueltas previamente en relación a este caso eusko jaurlaritza

jardungo du mantenemos por tanto firme

a colaborar con la justicia en aras a la pronta resolución del caso y una vez

este gobierno será consecuente con lo que dictamine

y actuará en consecuencia mientras tanto señora garrido continuaremos centrando nuestros esfuerzos en lo que constituye nuestra responsabilidad y prioridad máxima

consolidación del sistema sanitario de euskadi mi primera prioridad

y como me consta señora garrido que tiene usted una buena vista le invito de nuevo cuando baje a que mire esa fotografía haber si me encuentra

de la edad pero una sí tiene buena memoria y le puedo recordar que sé muy bien que es usted

suscribió esa declaración y está entre las diecisiete personas que firmaron esa declaración y si no salga aquí luego y lo desmiente pero usted sabe que firmó esa declaración

las actuaciones de la comisión de investigación y el trabajo que se estaba realizando en ese momento en la comisión

posteriores que usted ha realizado en relación a esta comisión de investigación y también al trabajo de la justicia

importante sobre todo teniendo en cuenta sus declaraciones y que no ha sido imparcial en esta cuestión incluso su propia relación y vinculación con algunas

acusadas y también por su vinculación por el entonces consejero de sanidad el señor inclán por cierto algo dicen bien las investigaciones y por eso se imputan

a los acusados por cinco delitos con penas es que no estamos hablando señor consejero de un episodio

de cinco delitos estamos hablando de cuarenta años de prisión estamos hablando de seis coma ocho millónes de euros de indemnización y estamos hablando de que el gobierno vasco

no ha presentado escrito de acusación presentando ninguna pena de prisión cero penas de prisión por lo tanto señor consejero un episodio puntual no hombre llama la atención

a hablar de respeto a la justicia cuando ustedes aquí trajeron una iniciativa o apoyaron una iniciativa en esta cámara que trata de interferir

hay que tener de verdad eso es coherencia política y desde luego convicciones en principios desde luego

cuando uno ve ya digo las manifestaciones que hace y las actuaciones de su grupo

cuando nos afectan a nosotros hay que dejar que la justicia

mire señor consejero y me voy a dirigir ya al señor lehendakari porque era al que iba dirigido esta interpelación yo lamento que usted

porque el que tenía que haber salir hoy aquí a dar la cara y explicarnos

usted es el que preside el gobierno que ha decidido no sabemos en base a qué el señor erkoreka nos decía que en base a ciertos informes jurídicos

los informes jurídicos como juristas qué casualidad que en estos asuntos siempre mantienen el criterio

sigue manteniendo el partido nacionalista vasco ya desde esos momentos en los que el propio consejero apoyaba esas declaraciones en las que negaba cualquier tipo

que los servicios jurídicos del gobierno vasco tienen un criterio radicalmente opuesto al criterio de la fiscalía en uno de los casos más graves de corrupción usted era señor lehendakari el que tenia hoy que haber salido hoy aquí porque es que la pregunta a ver cuál ha sido el propósito del gobierno para mantener esa discrepancia radical con la fiscalía al evitar la petición de prisión a los acusados en el conocido caso margüello

no lo ha explicado y yo creo que una persona que ha tenido

protegiendo a estar personas claramente están protegiéndolas porque ustedes con sus actuaciones se ha inhibido en el ejercicio de su responsabilidad que era haber solicitado o

la oportunidad de solicitar penas de prisión cuando la fiscalía solicita cuarenta años de prisión ustedes desde luego sabrán lo que hacen sabrán

que la sombra de la sospecha está ahí pero como estamos ante un proceso judicial que todos queremos que termine cuanto antes y la justicia

esperemos que este caso se esclarezca cuanto antes incluso todas

y se llegue hasta dónde se tenga que llegar eskerrik asko garrido andrea darpón jauna zurea da hitza

que había mentido al mirar la foto se lo repetiré nuevamente en el gobierno tenemos plena confianza en la justicia usted y yo por mucho que quiere interpelar en este caso al lehendakari urkullu sabe que no tiene nada que ver el criterio corresponde a los servicios jurídicos

yo soy médico no soy ningún experto en derecho y por ello ante una cuestión tan seria como esta para actuar con rigor debo apoyarme en el criterio de los servicios jurídicos de modo

con seguridad y con responsabilidad institucional insisto insisto el gobierno es el primer interesado en que esta cuestión se juzgue y se esclarezca cuanto antes

a fin de poder solicitar el resarcimiento del posible perjuicio económico como he citado en la anterior intervención corresponde al tribunal

y si existiera cuantificarlo en todo caso

que usted ha citado que el fiscal alega como perjuicio económico

corresponden al importe total del conjunto de la prestación de servicios

no se puede dar por sentado dicha cuantía como si fuera un perjuicio económico en su totalidad dado que todos los servicios se prestaron en los términos contractuales acordados

no es una opinión mía que no la tengo sino que los directores de la oficina de control económico de dos gobiernos sucesivos comparecieron en la causa

de semejante quebranto económico en sus declaraciones le voy a leer textualmente la afirmación los servicios contratados se realizaron en los términos convenidos y de conformidad con las tarifas establecidas y en el propio informe emitido por la oficina de control económico en el año dos mil diez se establece

el pago está justificado si el servicio se ha prestado efectivamente y el precio es el contractual es más el propio auto de la audiencia provincial de bizkaia reconoce que puede ser objeto de debate

un efectivo perjuicio económicamente evaluable para la administración pública quizás también convenga recordar en este punto

que viene a decir que incluso aunque se anule un contrato por defectos legales del mismo

por el contratista no puede pretenderse después no efectuar el pago correspondiente y no lo entiendo yo así lo viene entendiendo la doctrina del tribunal supremo

que todos los servicios se prestaron en los términos contractuales acordados sinatutako zerbitzu guztiak eman ziren kontratuan adostutako baldintzak betez con respecto a la declaración que varios cargos suscribimos en su momento

he de recordar que no se trataba de un manifiesto contra el procedimiento judicial ni siquiera de un manifiesto a favor de los encausados sino de una declaración que reclamaba a la comisión de investigación transparencia responsabilidad y rigor porque se está asistiendo como usted bien conoce a filtraciones semanales de datos a los medios de comunicación cosa que ni debió suceder ni ayudaba a la investigación

tan es así que el propio ararteko en su resolución del cinco de julio del dos mil diez concluyó que había

de los indicios de irregularidades existentes nota que obliga a introducir especiales cautelas

en todo caso y para finalizar a riesgo de resultar repetitivo estamos ante un asunto judicializado dejemos a la justicia

ofrecer las explicaciones oportunas al respecto ni en el gobierno ni en el partido nacionalista vasco protegemos a nadie

que sean fuertes por mi parte como consejero de salud le puedo asegurar que la gestión de los recursos públicos

y rigor y que todas las contrataciones se realizan con exquisito cumplimiento de lo establecido en la ley de contratos del sector público eskerrik asko esperaremos la sentencia

baina ez duzuela plan oso bat oztopo horiei aurre egiteko estamos preocupados porque ustedes mismos sitúan en españa

en los tribunales politizados en una serie de problemas para llevar adelante políticas importantes para este país y sin embargo nos parece que no nos ponen sobre la mesa

de españa nos deja a la intemperie que no hay garantía ninguna de que el gobierno vasco se vaya a quedar sin las competencias que ya tenemos de la noche a la mañana y que vayamos a conseguir nuevas y sin embargo no tenemos refugio ante esta situación erkoreka jaunak batzordean iragarri zigun gobernuaren

sin duda una estrategia de respuestas y también una estrategia de propuesta

es necesario compartir un diagnóstico común y este es el objetivo uno

la propuesta de actualización de autogobierno debe realizarse en el marco plurinacional a pesar de la ausencia de un estado verdaderamente plurinacional

la historia nos ofrece la formula de los derechos históricos de los territorios forales también la garantía de bilateralidad a través del pase foral o de sobrecarta he planteado la idoneidad de su actualización articulando jurídicamente el aplazamiento de las normas dictadas

y aplicación efectiva planteo la actualización del autogobierno con la visión de la unión europea y un nuevo sistema relacional es necesario arbitrar formulas

también un nuevo sistema de relación político institucional entre el estado español y euskadi la inercia del debate sobre el modo o sobre el modelo de relación entre euskadi y el estado podría llevarnos a concluir que la principal necesidad a la que se debe responde en este momento es definir

y sin embargo yo creo que la ponencia de autogobierno de la que ustedes forman parte es el lugar en el que ha de sustanciarse todo el trabajo hasta llegar a la propuesta definitiva mientras tanto creo que se pueden seguir dando saltos cualitativos

reconocer la institucionalización como un proceso dinámico y gradual defender lo construido hasta ahora y reivindicar el cumplimiento integro de lo que por ley nos corresponde

sería un salto cualitativo pedagógico que permitiría demostrar que el interés de fondo es que euskadi mantenga su personalidad

y pueda progresar en su autogobierno y en la adquisicion de herramientas que fortalezcan sus capacidades de decisión y de interlocución esan dizudan bezala erronka berri honen aurrean

adostasuna nahi dugu bai adostasuna eta adostasuna landuko dugu el acuerdo que da soporte a este gobierno al que usted ha hecho mención destaca la prioridad de lograr más y mejor autogobierno una prioridad que vamos a defender con firmeza compartimos el objetivo de defender el autogobierno vasco ante el espíritu recentralizado del estado el objetivo de reclamar

demandar la transferencia de los instrumentos y competencias pendientes plazo tenemos el plazo de esta legislatura al tiempo que el trabajo en la ponencia de autogobierno defiendo con firmeza sí la bilateralidad como eje central de mi concepción del autogobierno la bilateralidad basada en el modelo de lo que es el concierto económico no comparto el menosprecio con que ustedes en general se refieren a la tarea de gestionar los límites del marco político jurídico actual

estado aquí la señora larrión quizá se habría basado en la justificación de la interpelación yo le aseguro que es una labor fundamental para euskadi significa garantizar la sanidad garantizar la educación garantizar las políticas sociales significa hacer

hacer política medioambiental y de desarrollo del territorio promover el empleo la cultura o el euskera mire la realidad de nuestro autogobierno es singular singular el futuro está abierto y acordemos su futuro eskerrik asko

participaremos y colaboraremos en ese debate desde la realidad en nuestra nacionalidad es decir desde el principio de nacionalidad

y reitero algo que ya he defendido con firmeza en este mismo parlamento es el momento de avanzar en un nuevo marco político de convivencia en euskadi

articule un pacto con el estado y sea ratificado por la sociedad vasca este es el objetivo expresado y alcanzable siempre y cuando renunciemos

primero nos corresponde defender el autogobierno conseguido de denunciar juntos la estrategia de recentralización del estado

que se ven sometidas a continuos recursos por parte del gobierno español nos corresponde preservar la capacidad política de este parlamento y defender las competencias propias segundo

es ley y como tal debe cumplirse en su integridad así lo han demandado con firmeza y rotundidad las y los consejeros en sus comparecencias ante esta cámara

y no es suficiente es muy importante recordar que fue la propia sociedad

y quiero hacer una apelación directa a la sociedad para que cobre consciencia y conciencia de que el estado está incumpliendo su decisión

en la defensa de nuestro autogobierno debemos aunar las fuerzas de las instituciones y del conjunto de la sociedad vasca para lograr el cumplimiento del mandato estatutario

solo de esta forma vamos a conseguir todas las herramientas del autogobierno y ahora avanzar y profundizar en el autogobierno adecuarlo

buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari

señorías mire señor lehendakari fue un shock un profundo disgusto

con el señor aurrekoetxea y otros miembros de su partido en sabin etxea

esos dirigentes de un colectivo

y en la reunión participaron esos directivos del pnv y

que como todo el mundo sabe fue condenado por trece asesinatos y muchos más crímenes

investigado por la justicia yo solo quiero recordarle su propio plan de paz y convivencia en vigor señor lehendakari las víctimas del terrorismo han considerado indigno el encuentro con uno de los etarras más sangrientos más sanguinarios

mantenido por el pnv en la sede central con el etarra lópez
ruiz kubati aquí no hay tolerancia cero señor lehendakari muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor barrio es una reunión pública que entra dentro de la normalidad de las relaciones que mantiene el partido nacionalista vasco con personas con instituciones

y yo no voy a entrar a valorar las reuniones que mantienen los partidos políticos o las instituciones si me pregunta por las reuniones mantenidas por el lehendakari

de este gobierno le contestaré con mucho gusto señor barrio yo respeto la opinión de las víctimas y creo que haremos bien en no polemizar en público sobre estas cuestiones en todo caso ha citado usted a dos personas que han sido condenadas y han cumplido ya sus condenas o sus penas por lo que según la justicia

civiles y políticos si usted tiene otros datos sería bueno que los pusiera a disposición de la justicia eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

gracias presidenta señor lehendakari la reunión pública sí

normalidad una reunión con el asesino kubati

kubati es la esencia de eta kubati es lo que representa

porque estamos hablando del plan de paz y convivencia de línea estratégica cuatro

que negociar con el asesino kubati cómo puede legitimar esas actitudes

que son públicas antes hablaba usted de respeto y dignidad en relación con una intervención anterior y eso es lo que debía controlar en este momento esas expresiones como esa reunión que causa dolor

a las víctimas del terrorismo y a muchos más vascos

nos causa dolor ver a kubati esa figura del horror y del crimen reunida partido político negociando qué señor lehendakari es decir no pudo usted parar una reunión con

la exigencia que todos creíamos que había que plantearnos en relación con eta es decir el suelo ético se está convirtiendo en alguna otra cosa de algún sótano ético yo le quiero decir

ahí están sus víctimas dolores gonzález catarain el historial es impresionante el electricista juan sánchez sierro uno de los peores atentados fue el cometido en san sebastián el cinco de octubre de mil novecientos ochenta y siete en el que asesinó a tres miembros de la familia garrido

a su mujer y al menor de sus hijos es decir qué hay que negociar

qué están negociando es decir eso señor lehendakari ha dicho la normalidad de las reuniones esa reunión no es normal kubati no se ha arrepentido kubati no colabora con la justicia

cometidos está siendo investigado las víctimas han dicho que es indigna ese tipo reuniones

mientras el partido popular no cambie su estructura organizativa donde uno es todo en el partido popular usted me haga la pregunta a mí en relación a una formación política en la que existe la bicefalia

o instituciones y pregunta usted qué tiene

dando por hecho que el señor kubati sigue siendo alguien que está perseguido por la justicia señor barrio yo insisto respeto esta reunión como respeto las que puedan mantener otros partidos políticos o instituciones

lo digo sabiendo como usted sabe que aplaudí y sigo aplaudiendo un diálogo que consideré y sigo considerando necesario señor barrio

entonces sí negociando no dialogando negociando ha hecho referencia al plan de paz y convivencia y me va permitir resaltar la actitud paradójica del partido popular en relación a los temas de paz memoria y convivencia en este parlamento

que no quieran dialogar y trabajar en la ponencia de memoria y convivencia y sí quieran

mire es su derecho señor barrio aunque yo no comparto su criterio porque no es fácil de comprender en cualquier caso lamento que hayan decidido no participar en la ponencia de memoria y convivencia que es el foro de diálogo y encuentro para avanzar

la memoria en relación al pasado y la convivencia futura yo les invito a dar el paso

les pido que reconsideren su decisión y participen del diálogo político pleno y normalizado en euskadi y le pido también que haga las preguntas que correspondan a quien corresponde

lehendakari jauna se cumplen ochenta años de los bombardeos que llevó a cabo el ejercito franquista sobre la población civil de bilbao como usted sabe bien concretamente comenzaron el veinticinco de septiembre de mil novecientos treinta y seis y se prolongaron

que desgraciadamente no han podido ser contabilizadas correctamente en ese contexto el cuatro de enero de mil novecientos treinta y siete

estaban presos por su supuesto apoyo a los golpistas lo que no quiere decir

mi pregunta concreta es por qué consideró usted

los bombardeos en el ochenta aniversario no era oportuno o no consideró oportuno hacer ningún tipo de declaración y en cambio el pasado cuatro de enero con motivo del aniversario

eskerrik asko señor hernández difícilmente el día veinticinco de septiembre del año pasado dos mil dieciséis

difícilmente señor hernández en cualquier caso he participado y participaré en todo tipo de actos de reconocimiento de la memoria histórica y de denuncia del alzamiento fascista y los crímenes del franquismo la declaración del cuatro de enero era importante dotaba de continuidad

usted habla del veinticinco de septiembre de dos mil dieciséis yo le recuerdo que dos años antes en noviembre de dos mil catorce ya en noviembre del año dos mil catorce el gobierno aprobó el programa base de prioridades en materia de memoria histórica y este primer programa o este

estructurado se presentaba con el objetivo de definir a partir del derecho internacional un mapa de actuaciones en materia de memoria histórica

así plan de búsqueda y de identificación de personas desaparecidas está realizado

está realizado el columbario de la dignidad para acoger los restos mortales de las personas desaparecidas sin identificar está inaugurado este lunes usted estuvo presente hoy reitero las ideas allí expresadas le cito

es un paso más en la recuperación de la memoria histórica representa lo que nos une por encima de lo que nos divide la sociedad vasca conoce el padecimiento inmenso de las familias

y oscuridad ha terminado no se preocupe señor hernández que participaré

y de denuncia del alzamiento fascista y los crímenes del franquismo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

es cierto que efectivamente el veinticinco hubiera sido complicado

la cuestión el objetivo de nuestra pregunta no es censurar su política respecto a la memoria histórica en la cual si es verdad que tenemos diferencias y yo he constatado en estos años ha habido una falta de sensibilidad en muchos aspectos con respecto a algunas asociaciones de memoria y respecto a algunas organizaciones históricas que participaron en la guerra pero ese no era el objetivo de mi pregunta el objetivo de mi pregunta era intentar comprender usted consideró oportuno a escribir ese artículo respecto a este hecho que nosotros compartimos que es condenable

así estos hechos sino que no comprendemos que se haga cuando esos hechos se dan en un marco más amplio y dentro de ese marco no se hizo

otro tipo de declaración de este tipo yo no he venido a censurarle que usted me dice aquí las cosas que ustedes parece ser que han hecho en

ni le he hablado sobre eso le he preguntado sobre ese hecho concreto porque no comprendemos que se hagan

porque está enmarcado en ese contexto más amplio de bombardeos indiscriminados contra población civil y echamos en falta que hubiera habido

de esta pregunta que nosotros le hacemos es verdad que el lunes yo estuve en la inauguración del columbario y es verdad también que sus declaraciones nos parecieron a mi grupo político y además lo he contrastado con organizaciones de la memoria histórica y también con el partido comunista al que usted sabe que yo pertenezco y nos parecieron acertadas

porque no recoge la opinión de todas las sensibilidades pero no era el objetivo este hoy mi objetivo como le digo era intentar comprender por qué usted consideró oportuno hacer esas declaraciones y no

de aquellos bombardeos que como seguro que usted sabe bien fueron asesinatos también criminales de mucha población en euskadi desde irún

la memoria histórica y a eso apelo a la memoria

yo la entiendo que es de todos es de todo es de todos y es para todos por lo tanto también lo del cuatro de enero también lo del cuatro de enero y la memoria histórica integral es un compromiso de nuestro gobierno

toda la memoria para todas las personas así lo hemos hecho y seguiremos haciendo durante todo este año dos mil diecisiete en que se cumplen ochenta año de entre otros acontecimientos también los que usted ha citado

localidades vascas también el año pasado el bombardeo de otxandio

el día dieciocho de junio de dos mil dieciséis ya participé como lehendakari en un acto de recuerdo organizado precisamente la víspera de la toma de bilbao por las tropas franquistas y esta semana como usted ha reiterado también con motivo de la inauguración del columbario

también las asociaciones memorialistas para recordar y honrar a todas y cada una de las personas represaliadas injustamente hace ochenta años siempre se puede hacer más

porque como dije también el lunes nuestra unidad es el mejor reconocimiento y reparación que podemos ofrecer
a su memoria y a eso me comprometo señor hernández eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

el gobierno es uno y actúa de forma colegiada y coordinada la distribución de funciones como usted ha recordado corresponde al lehendakari artículo siete de la ley de gobierno

de todo el gobierno no solo de un departamento y por mucho que estuviera la competencia de empleo junto con la de trabajo en un único departamento tampoco sería ese el departamento que trabajara

objetivo prioritario de todo el departamento y considerando precisamente la prioridad he decidido ubicar en el departamento de empleo y políticas sociales todas las

todas las iniciativas y todos los programas concretos dirigidos a favorecer el empleo me refiero a los programas orientados a las personas desempleadas la gestión de lanbide el empleo juvenil la formación para la inserción laboral los planes locales y comarcales

y por otra parte considero que las áreas específicas relacionadas con la seguridad laboral la inspección laboral y el diálogo social son materias con la suficiente entidad

ambos departamentos el de empleo y políticas sociales con el de trabajo y justicia como también otros como se demostró en el acuerdo del veintidós de julio con los departamentos entonces de desarrollo económico y competitividad y

ya que sus materias de actuación están relacionadas y esta es una ventaja para lograr el objetivo que compartimos reducir el paro

y es un objetivo insisto de todo el gobierno eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

en las que áreas y funciones relacionadas han estado adscritas a departamentos diferentes y la experiencia nos dice que esta situación no implica disfunciones y la responsabilidad de la coordinación es mía lo importante es el espíritu de colaboración la asunción de prioridades y el funcionamiento del gobierno como un órgano colegiado y le garantizo que esto está garantizado muy especialmente en el caso del empleo

veo por su pregunta que aún sigue especulando sobre la supuesta relación o supuesta vinculación entre el apoyo a los presupuestos generales del estado y los presupuestos generales

con fecha alguna para enviar el presupuesto al congreso de los diputados

un proyecto ni el señor rajoy ni el señor montoro han dicho nada al respecto no sabemos por tanto si presentarán al final el proyecto o intentarán buscar apoyos en uno u otros grupos parlamentarios para conseguir su aprobación

y optarán por una prórroga esa será su decisión ez dagokit niri jarrera bat ala bestea hartzea

en nuestro caso en el gobierno vasco tenemos la intención de traer el proyecto de presupuestos a este parlamento

con la firme voluntad de que sean aprobados en este cámara por una mayoría por lo tanto son proyectos diferentes con calendarios diferentes que se aprobarán en parlamentos diferentes por grupos parlamentarios diferentes y en momentos diferentes

la aplicación del ipc al incremento de la rgi haciendo caso omiso a lo indicado en la propia ley solo ha sido aplaudido por el partido popular y ha sido

quien ha avalado los signos de realismo que ve en este gobierno en relación a los presupuestos

que es fruto de un acuerdo no es más que la traslación directa de lo que el señor montoro ya había impuesto al resto de comunidades autónomas

un acuerdo con el partido popular un intercambio de apoyos con el partido líder en recortes dificultaría sobremanera los presupuestos sociales que necesita la ciudadanía vasca porque ustedes lo saben ustedes son conscientes la ciudadanía vasca no entendería que los presupuestos del gobierno vasco

de un intercambio de cromos entre el pnv y el partido popular a la aprobación de los presupuestos del estado unos presupuestos que no olvidemos influyen sobremanera

la lista es muy larga pero voy a poner unos pequeños ejemplos ofensiva contra los servicios públicos en esa estrategia tan propia de la derecha de llevar el sector público a su mínima expresión imposición del copago farmacéutico imposición de una reforma laboral que produce precariedad y trabajadores pobres una reforma de las pensiones que cada vez recorta más

una vida digna en definitiva imposición de un marco que nos asfixia de unas políticas de austeridad a ultranza que suponen no solo un freno y un obstáculo sino un ataque antidemocrático pues atan de pies y manos

y de desarrollar políticas públicas que tanto demanda la ciudadanía

que solo entiendo su insistencia desde una posición política escapista ahora da la sensación de que intentan buscar una disculpa ajena para desentenderse de un compromiso que a usted o mejor dicho a su grupo parlamentario le corresponde adoptar en esta cámara con los presupuestos

aurrekontuen aurrean nuestra intención como usted bien sabe es explicarles los presupuestos al máximo a todos y a cada uno de los grupos parlamentarios con el fin de buscar su apoyo a los mismos

en la comisión de hacienda hace escasas semanas quiero reiterarlo hoy aquí de nuevo queremos debatir con todos y todas ustedes discutir negociar

presentarse al proyecto además mi intención era y sigue siendo precisamente iniciar esas conversaciones con su grupo parlamentario

en la oposición hablaremos también por supuesto con elkarrekin podemos y con el partido popular

la labor del gobierno buscaremos el apoyo de todos y todas porque consideramos que es bueno para la economía y es buena para la ciudadanía de euskadi ya lo verá señora pinedo cuando traigamos los números y pueda ver

el norte no confundamos las cosas tenga por seguro que este gobierno vasco presentará

que sirvan a los intereses de euskadi y solo a los intereses de euskadi no quieran excluirse desde

para todos no al menos a las primeras de cambio desde luego nosotros no les vamos a excluir desde el gobierno eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

andrea señora tapia la semana pasada usted trasladó a los medios que se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de españa respeto a los accesos del tren de alta velocidad a las tres capitales vascas

en este sentido me permito indicarle que en vitoria gasteiz ya hay un acuerdo desde dos mil diez para el soterramiento del ferrocarril

que incluía la realización de un estudio de alternativas por la empresa prointec la firma de un acuerdo de colaboración entre cuatro instituciones y la constitución de una sociedad pública denominada alta velocidad vitoria gasteizko abiadura handia

y si se va a mantener la vigencia del citado acuerdo de colaboración pero además después de su anuncio por parte del alcalde urtaran se ha defendido ante los medios una alternativa similar a la propuesta en su momento por

que pasaría por soterrar una parte del trazado actual con un coste de cuatrocientos ochenta y cinco millónes o así lo hemos leído en los medios superior incluso

y querríamos saber si desde elkarrekin podemos nos gustaría saber si va a incluir ese trazado la imprescindible línea para el tránsito de mercancías también cuál ha sido el contenido de las negociaciones mantenidas con el gobierno central y cuál es el coste estimado de las alternativas que se están barajando

urtarrilaren hogeita seian izan genuen bilera madrilen izan zen bilera teknikoa eta aipatzen ditugu alternatibak qué queremos decir cuando hablamos de alternativas no está en ningún momento

para ganar espacios para la ciudadanía soterrando el tren de alta velocidad y aprovechando también para soterrar las actuales vías pero cómo llegamos desde donde está terminado el tramo en este momento a legutiano

desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista medioambiental

de cuál sea la alternativa más acorde sabremos cuál es el presupuesto que necesitamos para llevarlo a cabo eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea becerra jauna zurea da hitza

lo que me ha dicho usted es algo que ya sabíamos que hay que conectar con lo que ya está hecho que va a ir soterrado y que tienen que estudiar las alternativas lo que yo le he dicho es que ya hay un estudio de alternativa hecho en dos mil diez ya hay un acuerdo firmado de financiación lo que le he preguntado es

además usted me ha dicho que se prevé una vía alternativa para las mercancías y yo lo que le he preguntado es el soterramiento va a incluir las mercancías dentro de la misma estructura de la misma infraestructura

en el tema del tren de alta velocidad tenemos que decir desde elkarrekin podemos que los costes de los que se hablan son desmesurados desmesurados en el sentido de que entendemos

unos recursos económicos que no disponen las administraciones involucradas de ellos y que si se dedican por lo tanto va a ser de traerlos de otras partidas que posiblemente tienen mayor repercusión y mayor interés social

es por un lado el trazado efectivamente pero por otro lado los costes asociados al trazado

asumió el gobierno en su momento se van a mantener o no se van a mantener eskerrik asko becerra jauna tapia andrea zurea da hitza

no les preocupa tanto la alternativa de lo que va a ocurrir en gasteiz toda esta pregunta era para hablar de los costes los costes de la

algunos económicos pero también tenemos que ver los costes y los beneficios por cierto sociales

y cuando hablamos de qué nos va a costar a cualquiera de las administraciones vamos a tener en cuenta también y no nos vayamos a hacer trampas al solitario que esto es una infraestructura de interés general que abona el estado y que nosotros en el tramo guipuzcoano estamos adelantando y que lo descontamos del cupo vamos a llevar las cosas a su lugar correspondiente cuando hablamos de cuánto vamos a gastar para poner en marcha esta infraestructura señor becerra no cree que ya es hora de que euskadi

que no es hora de que nos conectemos directamente con navarra que no tenemos una conexión en condiciones no es hora de que tengamos una conexión rápida efectiva y eficiente

motivo de desarrollo económico de este país y por tanto de generación de riqueza

ya me está reconociendo que han intervenido tarde pero además han intervenido mal en primer lugar con su propuesta dejan de lado la situación de los treinta y nueve profesores y profesoras

y abocadas a la pérdida de sus empleos aquí realmente hay dos opciones mantener el proyecto educativo de la milagrosa tal y como está concebido a día de hoy que es lo que defiende la comunidad educativa que sustenta este centro y que piensa que solo hay garantías para el mantenimiento del proyecto

pero eso es evidentemente algo que se escapa de sus posibilidades porque hay efectivamente intereses privados por medio pero sí hay una segunda opción y es que en el caso de que sea imposible por no llegar a una concertación de esos intereses privados

a través de su plena integración en la red pública publificar el colegio de la milagrosa se puede hacer público el colegio en vez de hacerlo cachitos que es lo que ustedes están proponiendo porque donde había un problema van a generar

en el centro de rontegi y en el centro de minas también y les decía que les iba a explicar por qué estaba yo hoy aquí en lugar de mi compañera y es que además de ser se barakaldo donde

que es uno a los cuales se quiere desviar una parte de la población académica de los estudiantes de los alumnos del colegio de la milagrosa

de asumir el aumento de matriculación que supondría la llegada de centenares de nuevos alumnos es un colegio ejemplar en muchos aspectos

pero que si bien está dotado de muchas cosas que ha generado su comunidad educativa

estaremos juntos en la misma movilización no estamos contraponiendo un proyecto contra otro

de que todos estos proyectos se lleven adelante porque solo hay una opción

o bien se mantiene el proyecto de la milagrosa en las condiciones actuales o bien se le da una respuesta a las necesidades que existen desde

por tanto eso es lo que les estamos pidiendo que solucionen el problema

nuevos problemas en lugar de uno no lo multipliquen por tres no improvisen den una solución real hagan público si no hay otra opción el proyecto de la milagrosa para poder mantener en pie su proyecto educativo háganlo público y no lo hagan pedazos porque aquí hay muchas personas que creemos en lo público

y lo que no puede ser es permanentemente un foco de problemas en el cual tengamos que hacer dificultades que muchas veces incluso nos vienen dadas por parte

señor casanova hemos intervenido en el momento en el que nos han informado y en todo momento

kontuan izango da euren berariazko eskaera ahal den neurrian familien eskaerari erantzuna emateko la solución planteada por el departamento de educación se construye desde el consenso y además de tranquilizar a las familias asegurándoles desde el primer momento un puesto escolar en su municipio se contemplará adicionalmente la petición expresa de las mismas

nuestra prioridad es el alumnado y es en ese sentido que como responsables desde el departamento hemos adoptado y estamos adoptando las medidas excepcionales necesarias con todas las partes implicadas

del proceso de matriculación porque aunque solo tenemos constancia de la solicitud de cierre somos conocedores de que existen negociaciones por parte de alguna entidad por hacerse cargo del proyecto

gracias señora presidenta señor consejero la feria internacional de turismo fitur dos mil diecisiete se ha celebrado en enero durante las fechas dieciocho veintidós

la pregunta es señor consejero qué valoración hace usted de la agenda de las actividades que el gobierno tenía para dicha feria eskerrik asko

señora lópez de ocariz como bien dice fitur se ha consolidado como uno de los foros más importantes del turismo en el ámbito internacional y en esta trigesimoséptima edición ha batido récords de participación ciento sesenta y cinco países

fitur es por tanto un foro en el que hay que estar euskadi contó con un stand de setecientos metros cuadrados con ocho mostradores uno

de las capitales rioja alavesa montes y valles costa vasca y uno dedicado a un standarte de la marca euskadi basque country como es la gastronomía

actividades en las que presentábamos también la oferta turística en otro formato se presentó la campaña doce meses doce razones

la oferta del turismo familiar de álava entre otras además de otras iniciativas como la red de museos enogastronómicos o el congreso miniature

entre profesionales participaron ciento dieciocho empresas

de cuatrocientos ciento sesenta habían sido concertadas previamente

por último estamos realizando también una encuesta de satisfacción entre todos los asistentes a esas reuniones de trabajo y el personal que atendió los mostradores

el cincuenta por ciento de las respuestas con ese cuarenta por ciento decía las valoraciones son muy positivas en una escala del uno al cinco en todos los sitios que hemos contemplado en otras medidas superan los tres coma cinco puntos y la valoración más alta se refiere a la intención de repetir asistencia

con una puntuación de cuatro coma cinco en esa escala del uno al cinco por lo tanto la valoración que hacer de fitur es

muy positiva también lo es desde el punto de vista promocional por el impacto mediático logrado ochenta noticias publicadas en prensa treinta y nueve medios digitales

están los foros del conocimiento como usted sabe uno de ellos es fiturtech

para la incorporación de la tecnología en la cadena de valor turística algo muy importante en el siglo veintiuno para el turismo foro consolidado

concentraba la tecnología y la sostenibilidad ambiental bajo un mismo paraguas señor consejero su gabinete solicitó a la organización de fiturtech insistentemente un hueco para que usted

por el gobierno y haciendo encaje de bolillos los organizadores consiguieron encajar en la agenda del jueves diecinueve

y sostenibilidad ponencia euskadi como destino sostenible y experiencial alfredo retortillo consejero de turismo comercio y consumo gobierno vasco pabellón diez ifema acudió el público pero no acudió el señor consejero en su lugar alguien anunció al público asistente que el señor consejero

un premio premio que ya había sido entregado hacía dos horas señor consejero una chapuza en medio de mucho éxito pero una chapuza

mal con el público profesional que acudió a oír la ponencia una mala experiencia para el público profesional y para los organizadores

decía si no te ven no estás si no estás estás fuera y yo le digo si te comprometes que vas a estar y anuncias que vas a estar y lo justificas mal pues transmites una mala imagen y generas una mala experiencia y ese no es nuestro objetivo verdad consejero pues como no es nuestro objetivo esperamos que esto no se repita

el público profesional que acudió a escuchar esta ponencia recibió una mala experiencia usted sabe aquello de que has hecho cien no has hecho la ciento uno no has hecho ninguna al final

plantados yo señor consejero le animo a evitar situaciones como esta que no transmiten la imagen real ni la de usted

esa conferencia se organizó por insistencia nuestra como sabe ese tipo de conferencias son patrocinadas y nosotros ofrecimos ese patrocinio esa fue la razón por la que

de fitur incluyó la conferencia por el otro lado había un compromiso y el compromiso era que iban a estar además de mi persona en una de las ponencias

argentino de turismo y el representante

el representante de la puebla finalmente desapareció de la agenda no estaba para esa conferencia y el representante de argentina cambió del ministro argentino de turismo

esa fue la razón por la que declinamos la asistencia y finalmente no patrocinamos esa conferencia

egun on guztioi bien a la vista de la ley de creación del ente

el acto que protagonizó el pasado quince de diciembre el tertuliano habitual del programa qué me estás contando iñigo landa no se ajusta ni a los principios de la ley ni a la pauta de tratamiento de la información que el libro de estilo recoge este tertuliano rompió en directo una fotografía impresa que llevaba consigo del actual jefe del estado

lo que hace pensar que era una actuación meditada y preparada con suficiente antelación

de calentón o arrebato momentáneo en el acto de landa

que en protesta por la detención por los mossos desquadra de cinco jóvenes que habían quemado fotos del monarca

estamos hablando por lo tanto de una actuación que puede tener consecuencias jurídicas para quien la hace

hoy tampoco la actuación del señor landa contratado a dedo por el pnv en el ayuntamiento de bilbao y que en fechas recientes

de bilbao por su mal hacer que llevó a la queja de los propios agentes de esta policía local pero hoy no hablamos aquí como le digo en el parlamento de esa supuesta ilegalidad

de la responsabilidad de la cadena pública e i te be y de su responsabilidad señor consejero para que los principios legales y el buen hacer de la cadena reconocidos

se cumplan por eso le pregunto le parece que actuaciones como esta respetan el pluralismo político la promoción

y respetan el honor y la fama de las personas con qué criterios va a actuar en el futuro para impedir que algo así un ataque a una institución del estado se vuelva a repetir en

esan zizun bezala qué me estás contando programaren gidoian

del señor landa no mereció ni el reproche del presentador

ni fue puesto en cuestión por la directora de e i te be ni tampoco que usted haya tomado medidas para corregir esta situación lejos de todo esto como usted ha dicho el señor landa ha vuelto a los programas de e i te be a pesar de unos hechos que a nosotros lo dijimos en el consejo de e i te be consideramos graves en lo que puede parecer

para hacer actos como estos en cualquier otro programa romper la fotografía

incumple de manera clamorosa lo que se espera de una cadena pública pagada con el dinero de todos los vascos que forma parte de una red pública española como es forta y que debe ser un principio activo

la actuación del señor landa contradice de principio a fin los principios legales

una excusa para violar las leyes ni para admitir ataques contra símbolos del estado de derecho contra figuras institucionales de primer orden se imagina que yo hoy aquí sacara una foto del señor urkullu y la rompiese o que en etb se rompiese una fotografía de

o que se rompiese una foto de nuestra bandera sería inadmisible sería inadmisible que en una cadena pública

pues muy bien etb puede no ser culpable de lo que hagan en un plató de televisión

pero sí es responsable como lo es usted señor consejero de que la cadena vele por el cumplimiento de la ley

por ser un agente activo en la defensa de los valores y principios democráticos esperemos que así lo haga porque hasta ahora

usted quiere que yo comparezca aquí y le diga que e i te be no volverá a convocar al señor landa a un programa de opinión ni en la televisión ni en la radio

ni quita tertulianos afortunadamente por lo menos no el gobierno vasco no sé si otros lo harán si cree usted que en e i te be debe haber algún veto sobre alguna persona sobre algún comportamiento y es capaz de precisarlo le invito a que como miembro del consejo de administración de e i te be lleve una propuesta a ese órgano y lo someta a votación de sus miembros

yo tengo un respeto tremendo por los profesionales que dirigen este tipo de programas porque

y una parte importante de sus programas son las personas que por su buena voluntad y por su compromiso personal o profesional acuden a ellos a dar su opinión y hacer posibles sus programas

y profesional le voy a confesar que nunca he sentido la necesidad de romper la fotografía de nadie

pero bueno cada uno asume la responsabilidad de sus actos yo siempre lo he hecho y espero que el señor landa si fuera el lugar o si fuera el caso pues también asuma esa responsabilidad cuando yo he estado en programas de opinión nunca me han preguntado lo que iba a hacer nunca me han preguntado lo que iba a decir nunca me han censurado una opinión o me han llamado la atención sobre lo que haya podido decir

en declaraciones anteriores a las de hoy usted ha hablado de hechos delictivos

al acto del señor landa creo que debería tener usted más cuidado y no hacer declaraciones que puedan limitar

y creo que deberían tener ustedes mucho cuidado señora llanos porque algunos comportamientos de su gobierno como son los sucesivos cambios del código penal o incluso la ley mordaza suponen límites muy serios